muchas gracias señora presidenta yo tampoco me voy a extender mucho porque este tema lo hemos debatido hace poco también en esta

lo que va a ocurrir que es poco más o menos que lo mismo que ocurrió hace menos de un mes si no me equivoco en el que llegamos a un acuerdo en una transaccional y básicamente vamos a volver a llegar a ese acuerdo yo solo quiero decir

portavoz que nos trae la iniciativa sobre kutxabank pues que efectivamente kutxabank ha llegado a un acuerdo con los empresarios para financiar a las empresas usted se contradice un poco

hombre podríamos considerar obra social que kutxabank diera prestamos a interés cero y que no ganara dinero

entonces díganos usted exactamente qué es lo que está planteando porque también podríamos considerar obra social prestar a los empresarios el dinero de kutxabank al cero por ciento de interés por ejemplo díganos qué quiere

de qué se queja en este caso en el acuerdo al que se ha llegado en fin a los empresarios les parece bien y lo novedoso de ese acuerdo es que kutxabank

es que va a destinar ochocientos cincuenta millónes de euros para esa función para la financiación de empresas

como les ocurre a casi todas las instituciones financieras que les es más rentable y ganan más dinero financiando a las administraciones públicas comprando la deuda que emiten y por lo tanto

los que se quedan sin liquidez o sin poder acceder al crédito pues además de las empresas son los ciudadanos

en esta materia es decir ustedes son los que plantean que hay que emitir mucha deuda y además no pagarla por lo menos aquí en gipuzkoa sí la pagan y además dice que hay que pagarla pero aquí plantean lo contrario y todo eso que usted plantea se les llena mucho la boca hablando

que el banco desaparezca porque un banco que no gana dinero primero no puede destinar nada a la obra social

yo no sé que el otro día también en una comisión tuvimos el mismo debate o sea kutxabank hoy tiene los mismos dueños que tenían las tres cajas

los mismos los mismos dueños la bbk la kutxa y la vital son los mismos dueños

y por lo que nosotros sabemos la intención de los tres dueños es seguir siendo dueños de ese banco

y luego usted nos dice que claro es que es un desastre esto de cumplir las normativas que vienen de europa y de españa pero usted quiere funcionar

aquí por que es que sino no podría funcionar o cumple las normativas que vienen de bruselas

o usted no puede operar como banco decídanse qué quieren está muy bien decir que todo está muy mal no aportan absolutamente nada se contradicen y por lo tanto pues lo mismo que hicimos la semana pasada en la comisión y lo mismo que hicimos en este pleno hace

buenos días señor lehendakari la moción de eh bildu digamos que es un

parlamento de una iniciativa del mismo grupo relativa a asegurar el vinculo de kutxabank con su territorio debatida en este pleno el pasado día veintiuno de marzo y de otra iniciativa del mismo grupo relativa al mantenimiento y fortalecimiento de la obra social de kutxabank debatida

pleno y ahora eh bildu nos propone una especie de mix un sumatorio de ambas

que desarrolle determinadas políticas públicas a garantizar también la obra social

original nosotros hemos planteado una enmienda para que este parlamento diga que cree indispensable garantizar

de kutxabank como vía pensamos más apropiada para el desarrollo y el cumplimiento de sus objetivos y funciones entre los que efectivamente se encuentra

que ayude al desarrollo económico y social del conjunto de la sociedad respecto a las enmiendas del grupo popular y del grupo nacionalistas vascos lo cierto es que

ya han planteado en este mismo parlamento y a partir de ahí nuestra transaccional en la línea de lo que ya se aprobó aquí hace unos meses con la inmensa mayoría del voto de los grupos en fin podemos hablar de este tema largo y tendido yo únicamente diré algunas cosas decía el señor isasi

sí que en su intervención del día veintiuno de marzo que esta crisis tiene un origen y unos responsables que evidentemente debemos buscar en las entidades financieras

literalmente hace unos meses y yo quería decirle que esto no es exactamente así los responsables de la quiebra de un gran número de cajas de ahorros

fueron los partidos políticos que ocuparon y privatizaron las cajas de ahorros para ponerlas a su servicio lo que llevo a su quiebra

partidista por parte de los diferentes partidos políticos de las diferentes cajas de ahorros para ponerlas a su servicio y de ahí ocurrió lo que ocurrió y que todos conocemos y lo cierto es que la politización de las cajas de ahorro españolas es un hecho creo que incuestionable en los últimos tiempos y esa politización

que estas entidades han tenido con el coste que ha supuesto para el conjunto de los ciudadanos y para el erario público rescate incluido las cajas de ahorro politizadas contribuyeron a financiar la última fase de la burbuja inmobiliaria financiaron proyectos regionales absolutamente disparatados que no tenían ningún sentido concedieron créditos arriesgados a empresarios afines

y condonaron deudas a los partidos políticos esto es básicamente lo que un gran número de cajas de ahorros españolas han hecho durante los últimos años además emitieron las preferentes y nosotros nos hemos

a todas estas decisiones que ya digo han pretendido anteponer los intereses de unos pocos a los de la mayoría de la sociedad y ahí están por ejemplo las querellas planteadas por upyd la querella bankia

de las preferentes entre algunas otras por ello nosotros hemos venido defendiendo y seguimos defendiendo la despolitización de las cajas de ahorros y su profesionalización

lo defendimos también en este parlamento en varias ocasiones en varias iniciativas y lo defendimos también en este parlamento cuando se debatió se votó y se aprobó la actual ley de cajas desde luego es cierto que las cajas de ahorros vascas han estado mejor gestionadas

defender y alcanzar esos objetivos y principios de máxima profesionalización y máxima despolitización de las entidades financieras en fin se trata de recordar lo ocurrido en el pasado e impedir que vuelva a suceder

del año dos mil doce bbk kutxa y vital trasladaron su negocio financiero a kutxabank y son las únicas accionistas del nuevo

aquí se ha dicho en reiteradas ocasiones es decir kutxabank es un banco que tiene tres accionistas que son tres cajas de ahorros que son las que llevan a cabo la obra social

de los beneficios de kutxabank a más beneficio de kutxabank más posibilidad de que se desarrolle esa obra social y su principal cometido es gestionar

y nosotros queremos que se mantenga y se fortalezca la obra social y que a kutxabank le vaya bien para que bbk kutxa y vital puedan desarrollar

más obra social y que las fundaciones bancarias se dediquen a ello este ya digo que es un debate que puede extenderse todo lo que queremos pero para nosotros lo fundamental es esto en nuestra opinión sería conveniente desvincular claramente las fundaciones de las entidades financieras

y queden reducidas a lo que creemos que deben ser una especie de inversores institucionales

y a utilizarlos para la obra social un trabajo desde luego que es importante y que deben realizarlo de la mejor manera posible por lo tanto las fundaciones deberían priorizar la obra social este es su sentido último y las cajas de ahorros no deberían interferir en la gestión de las entidades bancarias y a partir de ahí ya digo nuestra

que las entidades financieras deben hacer funcionar el crédito absolutamente fundamental

y tome las decisiones de manera profesional y que pueda alcanzar los mayores beneficios posibles para que podamos dedicar también más recursos

en esa transaccional que nosotros hemos firmado con el partido popular y con el partido nacionalista vasco gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal abertzaleak taldearen

genituen kutxabank pide al gobierno facilidades para reabrir el grifo

una regulación estable para que pueda fluir el crédito a las empresas el plan de crédito a pymes suma los primeros apoyos con kutxa y laboral ipar kutxa kutxabank destina siete millónes a su plan para hacer frente a los desahucios kutxabank dará su apoyo a la política económica del gobierno

berregituraketa planetan kutxabank muestra a garitano su disposición a implicarse a salvar

kutxabank movilizará un total de ochocientos cincuenta millónes de euros en créditos

ha convertido a kutxabank en su particular jinete del apocalipsis por qué kutxabank si goza de la confianza de ciudadanía

un enorme compromiso con euskadi con nuestro tejido productivo

a qué se debe esta obsesión con kutxabank bildu está empeñado en desprestigiar y estigmatizar a kutxabank

con quien lo hace bien y va por el buen camino aplaudirle tener confianza y animarle a seguir como hasta ahora apoyando a nuestro tejido productivo eskerrik asko

porque aunque estamos en contra aunque la votaríamos en contra nos invita a hacer un debate en un momento en el que lo consideremos oportuno ahora que vuelve

jurídico y político del país vasco está bien ligar ese run run esos espacios genéricos

con los problemas de la vida real y con las cosas de comer y en este caso con un aspecto esencial para el desarrollo económico y social del país vasco como es el sistema financiero como es el sistema bancario el sistema público del crédito

a la economía social o ese servicio público en el que se tiene que convertir siempre el sistema financiero y en este caso kutxabank yo estoy seguro que cuando usted ha hecho la iniciativa la ha querido adornar y en realidad no ha querido venir aquí

sobre si este parlamento se tiene que pronunciar a favor de que kutxabank haga obra social porque es que hay unanimidad tiene que haber obra social otra cosa es

pero si usted pone a consideración de esta cámara

unanimidad si pone a consideración de esta cámara que kutxabank tiene que ayudar a las pymes unanimidad

si tiene que ayudar a la economía social unanimidad si tiene que ayudar a

unanimidad en fin no creo que usted nos quiera proponer hoy un debate de lugares comunes que sabe que sirven para la unanimidad sino que probablemente

solo en una frase de su moción y también en alguna explicación complementaria que aquí ha hecho cuando usted dice que hay que oponerse hay que obstaculizar este proceso de privatización cuando luego aquí añade que estamos perdiendo soberanía y cuando además dice en su exposición

en realidad estamos discutiendo eso estamos discutiendo desde la perspectiva del sistema financiero la autarquía estamos defendiendo algo que efectivamente tiene que ver con el estatus político y jurídico y con las contradicciones del nacionalismo

diga que euskadi es autosuficiente en el sistema financiero económico y social y otro partido independentista hace cuarenta y ocho horas haya acordado con el partido popular en el senado sin además ninguna intervención que se sigue adelante con el proceso

de la unión europea para privatizar más y para hacer más del sistema bancario

un negocio que un apoyo o un aporte a la economía pública a la economía social a la economía productiva ese es el debate de fondo

como bailarinas se han ido de puntillas todos han buscado los espacios comunes y además algunos han entrado también en ese enredo nosotros obviamente con la

que han hecho ustedes estamos totalmente de acuerdo es que esa enmienda transaccional ha sido debatida discutida y acordada por los grupos de esta cámara

pertenece incluso casi todo eso a los principios fundacionales

en fin es que esto es lo que es de perogrullo y la verdad que venir al parlamento a hacer afirmaciones de perogrullo que ya saben que era un señor que a la mano cerrada le llamaba puño cuando en realidad

es el debate de fondo y es el debate de fondo que la independencia cuando la llevamos a los asuntos de la realidad

el independentismo trata de fugarse por alguna esquina una parte de él

porque no es posible no es posible que haya un sistema financiero

propio como dicen ustedes el de euskal herria no es posible

ahí está el problema ahí está el problema que euskadi no puede tener un sistema financiero propio

porque es deficitario no puede tener un sistema de sanidad y de educación y de políticas públicas que no sea general y que no sea solidario y que no sea complementario

de la atención a la ciudadanía

euskadi como mucho que también es otro de los run runes puede tener una cierta soberanía alimentaria es decir todos podemos beber vino hasta aburrirnos

pero salvo en el vino yo creo que tenemos muchas dificultades para encontrar espacios de verdad de progreso espacios de verdad de esta sociedad que se puedan hacer desde la independencia que se puedan hacer desde esa euskal herria y desde esas ensoñaciones nacionalistas hombre

haya traído aquí este debate que haya puesto además ese acento

la vida real la vida pública la vida de las cosas de comer pues tiene otras exigencias si queremos tener recursos si queremos tomar dinero si queremos tener un dinero que públicamente se tiene que poner a disposición de las necesidades económicas y sociales de una sociedad

un sistema económico interdependiente y otra cosa es que hay que cambiar y hay que reformar cantidad de proyectos o de leyes

sobre las cuales quien está dominando y quien se ha posicionado en el control es las políticas conservadoras es evidente que detrás de algo que funcionaba en este país en algunos casos cuando digo este país ahora sí me estoy refiriendo al país vasco aquí teníamos tres cajas que

que han estado haciendo una política muy relacionada con los problemas de su sociedad pero que inmersas en una remodelación de un sistema bancario que lo que ha buscado es quitar esa parte pública del sistema financiero y del sistema económico y del sistema social para convertirlo en negocio

y eso es lo que hay que cambiar eso es lo que hay que reformar pero para eso necesitamos

y para eso necesitamos otra política europea y para eso lo que sobra es política de independencia

señor lehendakari que al final tiene que ir a madrid a pactar esto en función de las directrices de bruselas

y menos historias y a las cosas de comer seriedad y rigor y desde luego euskadi es un país es una comunidad

que queremos que mejore y que progrese pero que solamente es posible en ese marco de la autonomía en ese marco del autogobierno en ese marco constitucional y en ese marco europeo del que nos sacaría

tomen nota no solo para lo de hoy que se resolverá con ese pase

para cuando tengamos que seguir debatiendo sobre el nuevo estatus jurídico y político sobre el derecho a decidir sobre la consulta sobre tal

nunca a la hora de la verdad a ninguna parte que no sea el tensionamiento de la vida política pública y social de nuestro país

muchas gracias señora presidenta señor isasi nos decía usted que no era lo mismo el santander que caja

a los desahucios de kutxabank y de santander quizás debiera mirar en el ranking de entidades

y a lo mejor descubría que ni eran kutxabank ni era el santander

muy social y también tendré que recordarle que es una entidad privada porque dentro de su discurso entre lo privado y lo público me parece a mí que usted no lo tiene muy claro nos dice usted que

porque se lo he oído decir y luego nos viene a decir que es que ustedes lo que quieren es recuperar

para la sociedad no sé exactamente para qué supongo que para sus prioridades

qué se le ha dado y quién si es usted capaz de explicármelo o de explicárnoslo a todos y luego nos ha salido con su

mire yo de verdad ustedes quieren tener un banco público

háganlo si se lo dije el otro día solo es cuestión de poner dinero coger una ficha bancaria y hacerlo por ejemplo dependiente de la diputación de gipuzkoa pueden empezar así y ponen ustedes su dinero y el de sus amigos

a ver quién invierte en ese banco porque va a ser muy social y muy fantástico por qué no lo hacen

vendan la participación que tiene por ejemplo kutxa en kutxabank

sálganse de ahí y apliquen el dinero a crear su banco público que va a ser fantástico nosotros no se lo vamos a impedir

a ver cómo funcionan y a ver que bien va y a ver cuánta obra social hacen

pero a la hora de la verdad poco o nada por lo menos desde donde gobiernan

sí presidenta señor isasi si este debate

usted hubiera perdido la silla porque si no se ha atrevido aquí a defender la independencia y la soberanía del sistema financiero cómo le iba a defender en sevilla allí hubiera perdido la silla y la voz y la verdad es que

y en esta incapacidad de defender ese nuevo horizonte ese horizonte que nadie sabe dibujarlo que nadie sabe cuál es

con el asunto del soberanismo vengamos a esta cámara a hacer un debate político de fondo que es lo que tendríamos que hacer para ver las ventajas llevadas

a la política diaria de esa soberanía y de esa independencia y que usted

la moción que ha traído porque no ha sido capaz de defenderlo y vamos a votar a favor de la enmienda transaccional porque nos encanta también ver al partido nacionalista vasco otro partido independentista

en ese encuentro con los españoles en ese encuentro con la reforma una y otra que propone el gobierno de rajoy

verles ahí nos encanta saber que detrás del nuevo estatus

hay humo hay ruido pero no hay consistencia no hay nada para la ciudadanía vasca no hay progreso y no hay futuro y claro si ustedes nos brindan la oportunidad

ustedes que vamos a hacer les vamos a aplaudir hasta con las orejas muchas gracias

muchas gracias señora presidenta señor lehendakari señorías hoy vamos a hablar del tren de alta velocidad

sin ninguna intención de convertirlo en un debate manido todo lo contrario lo que pretendemos es que las instituciones competentes tanto el ministerio de fomento como el gobierno vasco

como la infraestructura más importante de la historia reciente de euskadi a estas alturas de la película todos tenemos conocimiento que las obras de la y vasca están pasando por sus peores años en dos mil doce

un cuarenta por ciento sobre lo consignado dejando la asignación en ciento noventa millónes para las obras de su competencia

nos encontramos con que el gasto ejecutado en las obras habrá sido de noventa millónes de euros es decir el cuarenta y siete por ciento de lo previsto los socialista vascos vemos con preocupación

así como las incertidumbres que se han abierto en los últimos meses el gobierno central

del congreso para hablar sobre el tren de alta velocidad no concreta los plazos en los que prevé la finalización de lasobras es muy preocupante para los vascos cada vez vemos cómo la y vasca se está alejando más de los intereses ministeriales y desde euskadi

las empresas adjudicatarias de las obras denuncian la paralización de los tajos porque a comienzos del dos mil trece adif les advirtió que debían trabajar al quince por ciento de su capacidad porque no había dinero para pagar más el ministerio de fomento alega que no se puede cumplir con la inversión prevista por la imposibilidad

esta justificación desde euskadi no la podemos admitir o por lo menos los socialistas vascos no la vamos a admitir porque esta falta de financiación no ha afectado a todos por igual de hecho hay territorios a los que no solo les han cerrado el grifo

la inversión véase al caso del corredor de alta velocidad entre valladolid y burgos donde había consignado ciento veinticinco coma cinco millónes de euros

ha acabado gastando ciento ochenta y cinco millónes en resumidas cuentas

se han incrementado casi en un cincuenta por ciento más de lo previsto en ningún momento vamos a criticar porque sería de necios el criticarlo esta inversión juega a favor de los intereses vascos

la conexión ferroviaria de euskadi con madrid lo que queremos demostrar con ello es que el argumento de la financiación de adif no es un argumento válido

pero podemos poner más ejemplos con los que demostrar que es mentira que la y vasca es una prioridad para el ministerio de fomento

los vascos no podemos aceptar cualquier cosa y quedarnos callados como leímos en presa el otro día el departamento vasco de política territorial

para evitar enfrentamientos con madrid señorías el estar callado es aceptar que lo que está haciendo el ministerio de fomento está bien no lo podemos consentir las obras de alta velocidad a galicia para nada han tenido que ver reducida la inversión al mismo

solo se ha recortado un diez por ciento y en ourense el gasto ha sido de un veintinueve por ciento inferior a lo previsto para nada comparable con la reducción

sin olvidar el recorte que sufrimos en dos mil doce en estas obras la ministra sí se moja será porque es gallega el mes pasado se comprometió a que la conexión con madrid estaría para el dos mil dieciocho

a la señora pastor que las obras de alta velocidad a galicia no están integradas en ningún corredor prioritario para europa cosa

sí la comisión europea comienza a estar preocupada por los ritmos constructivos que lleva adif especialmente considera que existen tres tramos problemáticos y qué casualidad

son gestionados por el ministerio de fomento por eso hoy los socialistas presentamos esta proposición no de ley por la que pretendemos que el parlamento vasco inste al gobierno de españa

la comunidad autónoma del país vasco y adif para la construcción de la nueva red ferroviaria para el país vasco suscrito el veinticuatro de abril del dos mil seis y actualmente en vigor haciendo la encomienda extensiva a la totalidad de los tramos de la y vasca

con el objetivo de que todas las obras de plataforma de toda la red en el país vasco estén concluidas antes de finalizar el dos mil dieciséis al ser gestionadas por el gobierno vasco

de nada sirve que el gobierno vasco asuma la gestión de tramos vizcaínos y alaveses

de la misma forma que está ejecutando los guipuzcoanos la consejera no me entendió la pregunta que le hice o no me quiso entender pero sin ningún problema se la hemos vuelto a hacer de una forma más concreta y por escrito para que nos la pueda contestar

cuánto se va a ejecutar en el dos mil trece eso es lo que queremos saber los socialistas vascos

es que en el año que lleva el pnv en el gobierno

igual que está haciendo el ministerio como dije la semana pasada en esta tribuna

un año incluso algunos se han retrasado en dos y esto porque

establecidos en el presupuesto del dos mil doce del gobierno socialista

andoain urnieta urnieta hernani hernani astigarraga son tramos que han tenido que ver cómo se han retrasado por el actual gobierno vasco y nos interesa que los tramos estén finalizados cuanto antes para que así adif cuanto antes también se ponga en marcha

ayer a la ministra de fomento que en enero de dos mil catorce adif ya va a comenzarlo pues cuanto antes estén terminados los tramos antes podrán finalizar la colocación de las superestructuras como he dicho anteriormente

a apoyar al gobierno vasco para que reclame al gobierno central la ampliación de la encomienda de gestión dos mil seis

por el gobierno vasco vía cupo pero siempre y cuando el gobierno se comprometa a ejecutar en tiempo y forma

sino los tramos que vayan a asumir vizcaínos y alaveses como por ejemplo

visto si al final acaba siendo asumido por el gobierno visto lo que dijo ayer la ministra pastor en su interpelación en el congreso

que trabaje para la ejecución de los tramos guipuzcoanos en tiempo para que los tramos vizcaínos y alaveses sean incluidos en la encomienda de gestión dos mil seis y estén finalizados en el dos mil dieciséis los socialistas vascos con esta proposición no de ley

al gobierno central que presente en dos meses un plan detallado de inversiones con fechas de licitación y de finalización para las obras pendientes de plataforma

ave entre vitoria y burgos así como entre pamplona y la y vasca todo ello al riesgo de que la y vasca

sin conexión con madrid por la meseta castellana como parte fundamental del eje atlántico europeo hasta la frontera francesa y sin conexión con el eje mediterráneo

que únicamente conecte las tres capitales vascas

se comprometa con ella de la misma forma que lo está haciendo con otros trazados y sinceramente no tenemos claro las conclusiones de la pasada reunión

con el fin de analizar el desarrollo de la construcción de esta obra por un lado salen noticias diciendo que fomento aparca por ahora la alta velocidad

con la colocación de un tercer hilo para nosotros entendemos que es una forma de penalizar a euskadi porque vamos a tener problemas en tiempos de viajes de mercancías y también de viajeros por otra parte podemos leer que el ministerio rectifica

será a través de alta velocidad en el caso de que haya dinero incluso dentro del propio gobierno vasco hay voces discordantes al tema el portavoz del gobierno el señor erkoreka

que fomento dejaba sin alta velocidad el tramo de burgos vitoria

fuera en alta velocidad ayer la ministra de fomento en su intervención en el congreso parece que negó

sin alta velocidad que vaya a ser establecido un tercer hilo a través de la línea de adif pero la verdad que hoy nos encontramos

ofrece al gobierno licitar las obras de que la ministra no ve enfría la petición vasca de licitar el nudo del tav en bergara por todo ello no tenemos nada claro al respecto y hemos solicitado la comparecencia

a fin de que explique y exponga en primera mano ante la comisión los temas que se trataron en dicha comisión

porque en definitiva no podemos estar en esta incertidumbre

o conversiones contradictorias como décimos en nuestra proposición no de ley necesitamos que el ministerio de fomento se moje también a este respecto y sea claro detallando las inversiones para la conexión con la meseta y con pamplona porque en definitiva señorías la y vasca no solo es una inversión para los vascos y para las vascas

es una inversión un proyecto estratégico para euskadi para españa y para europa

esta iniciativa que hoy debatimos también se ha presentado en el congreso pero por el partido nacionalista vasco eso sí con una enmienda del partido socialista que complementaba el texto y lo hacía idéntico tan idéntico que me hace dudar de quién es realmente la iniciativa que hoy debatimos

señor zaballos el otro día usted preguntaba y criticaba a la señora consejera

pero al mismo tiempo y a pesar de ello usted anunciaba que hoy

realizada por el gobierno vasco se extendiera a todos los tramos de la alta velocidad vasca cierta incoherencia

es lo que toca criticar la gestión del gobierno del partido popular

tienen el tejado de cristal y hay que tener cuidado con las piedras que uno tira por otra parte pienso que usted no tiene mucha confianza en que su partido el partido socialista

porque si no quizá usted no pediría ese trasvase de la encomienda al gobierno vasco digo yo señorías en la primera respuesta

decía el gobierno vasco no realiza ninguna aportación a las obras del tren de alta velocidad

puesto que estas obras son financiadas en su totalidad por el ministerio de fomento del gobierno de españa

de interés general del estado y un corredor de transporte prioritario europeo

hay que interiorizarlo y expresarlo una vez más con rotundidad el gobierno vasco señorías no realiza ninguna aportación a las obras del tren de alta velocidad todo lo paga el gobierno de españa más fondos de la unión europea porque a la hora de hablar de dinero presupuestado invertido en el tramo guipuzcoano o en los otros al fin y a la postre es la administración general del estado la que paga

señorías por su importancia por su envergadura

en esta cámara y tiene una historia en la que todos nos hemos retratado la historia de la modernización de euskadi la historia de una infraestructura que nos va a conectar con europa y nos va a

que ha superado muchas muchas dificultades económicas presupuestarias y lo que es más terrible atentados terroristas porque la trágica historia de este país es que eta ha asesinado a gente también por el tren de alta velocidad

hace cinco años por el mero hecho de ser un empresario

y al desarrollo de euskadi por participar su empresa en las obras del tren de alta velocidad así de terrible

así de criminal y la historia de esta infraestructura ha tenido además este crimen incalificable muchos avatares porque en el gobierno del señor ibarretxe esta obra estuvo prácticamente parada porque el señor madrazo que gobernaba por el pnv en cuyo partido estaba usted señor matute se acuerda no quería la y vasca no se sabía si apostaba por una o o por una décimo o por una u resultado una paralización de años

sino por razones estrictamente políticas pero ya que estamos haciendo historia fue un gobierno del partido popular el que aprobó en el año dos mil el estudio informativo

pero la llegada del partido socialista señorías al gobierno hizo que esos tramos licitados se paralizaran

cuando llega el partido popular al gobierno o sea hace solo dos años

tanto las que realiza adif como las del gobierno vasco se habían iniciado pero quedaban señorías por ejecutar más del setenta y dos por ciento de la inversión y lo que es peor no estaba garantizada la financiación

se habían prometido hacer cosas es verdad pero sin dinero y la planificaciónera

prometer hacer las cosas sin dinero o con dinero prestado la verdad es que es bastante fácil

ni prometiendo plazos avanzar decididamente en la implantación de la alta velocidad en el país vasco

que esta infraestructura es prioritaria para el gobierno del partido popular y ustedes tampoco

datos en el dos mil doce se destinaron más de setecientos cuarenta millónes de euros a las infraestructuras de transporte vasco

directamente una inversión de casi trescientos noventa y cuatro millónes de euros y de esa cantidad a la y vasca se dedicaron trescientos siete millónes además en el ramal guipuzcoano trescientos cuarenta y siete un poco más con cargo al cupo y por tanto financiados

el dos mil trece contaba con trescientos quince coma siete millónes de euros de los que el setenta y cinco por ciento eran para el ferrocarril y ciento noventa para la y vasca

ese dato todavía no lo tenemos porque usted sabe bien que tiene usted una respuesta de la señora consejera del tres de diciembre

esto es en estos dos años de gobierno del partido popular se están destinando mil cuatrocientos dieciocho millónes de euros

el tejado de cristal que le comentaba señor zaballos inversión en ocho años de gobierno del partido socialista del señor zapatero mil millónes de euros inversión en dos años del gobierno de mariano rajoy

casi la mitad de la inversión ejecutada hasta este momento y en estos presupuestos en los del dos mil catorce

que son efectivamente una cifra similar a la que ha habido en el dos mil trece

que demuestran que no se reduce el esfuerzo a pesar de una coyuntura dificilísima y que se mantiene ese esfuerzo es verdad que el gobierno vasco ha presupuestado trescientos cincuenta millónes pero también es verdad

los cincuenta y uno millónes de euros que ha aprobado la comisión europea las buenas expectativas de que el corredor ferroviario atlántico

con el gobierno de francia para que la conexión sea no como dijeron

sino para adelantar la fecha que a todos nos asustó del dos mil treinta y hay un compromiso por escrito del gobierno francés en el que francia ofrecerá una solución para poder enlazar el tren de alta velocidad en euskadi

señorías ustedes piden dos meses que se elabore un plan detallado de las inversiones pendientes y eso es lo que está haciendo el gobierno de españa la comisión de seguimiento

por cierto es la primera vez que se reúne desde el dos mil seis más de siete años de inactividad

desde el dos mil seis hasta el dos mil once qué ocurrió pues ahora sí

se va a reunir como usted bien sabe en enero de nuevo para tratar los temas del acceso a bilbao y a san sebastián a bilbao el otro día san sebastián

objetivos e incuestionables y creame que el decir que es una obra prioritaria para el gobierno de españa

redundancia una reiteración porque frente a las enormes dificultades financieras se sigue invirtiendo

con enorme esfuerzo con voluntad política decidida con acuerdos y encuentros entre el gobierno de españa y el gobierno vasco porque la y vasca señorías es un acuerdo compartido entre gobiernos

que a algunos ya les gustaría pero eso no va a ser así va a estar

con el resto de españa muchas gracias eskerrik asko iturmendi andrea

en el congreso de los diputados sobre la problemática del tren de alta velocidad en euskadi concretamente de una moción consecuencia interpelación realizada por la señora sánchez robles y motivada por los

en las actuaciones del ministerio de fomento en euskadi en esta materia

y respondida por la señora ministra en los términos que aparece hoy en ciertos medios de comunicación

el día anterior a la presentación por usted señor zaballos en este parlamento de la iniciativa que ahora debatimos

aseveraciones efectuadas por el proponente en esta iniciativa entre otras cosas porque la verdad no es patrimonio exclusivo de nadie señor zaballos

incluye argumentos utilizados en la moción a que me refiero y en la parte propositiva usted transcribe el resultado de la enmienda transaccionada sobre iniciativa de nuestro grupo en el congreso de diputados por eso la vamos a apoyar recordar también que tales propuestas realizadas por nuestra representante en el congreso de los diputados pactadas posteriormente con otros grupos entre ellos con el

fueron rechazadas merced a la oposición mantenida por el grupo popular al respecto y decir también que la oposición a esta iniciativa también se opuso el grupo amaiur como aliado

decía inicialmente que la iniciativa me produjo una cierta perplejidad no tanto

y con cuyo contenido por cierto coincidimos plenamente como por venir suscrita por quien venía por el grupo socialista

el desarrollo de la red de alta velocidad española en ningún caso ha respondido a un ejercicio ordenado de jerarquización priorización y planificación sistemática basada en criterios objetivos

ajeno a los criterios marcados por la unión europea y al interés general ha provocado importantes ineficiencias y lo que es peor aún

ello sea así resulta cuanto menos chocante por no decir contradictorio

prefiero ser benevolente y quedarme con la idea que se trata de una cierta reflexión y aprendizaje de lo ocurrido por aquello de que reconocer errores del pasado o que rectificar es de sabios

lo lógico es que se realice por el norte de la península con francia

y también por otra razón porque el ancho de la red española es el que debe adaptarse a la europea y no al revés

desde francia sin embargo la primera decisión adoptada por el presidente gonzález la elección de la línea madrid sevilla como la primera para la implantación del ave en españa no deja de sorprender porque esta vía no era

la infraestructura además supuso crear en este caso sí una isla de alta velocidad por haberse

en lugar de conectar con el ancho internacional existente en alguna de las conexiones con francia

para llegar desde la península hasta paris bruselas y el norte de europa sin embargo se ha priorizado la alta velocidad hacia otras zonas madrid sevilla madrid valladolid valladolid galicia

la recientemente anunciada de unir ávila y segovia etcétera decisiones todas estas

responden a una lógica política de un estado radial mantenida tanto por el partido socialista como el partido popular

con madrid y ahora acabado el tiempo de los grandes fastos

ahora resulta que no hay recursos para la conexión con europa por euskadi por el camino más corto resulta que euskadi queda fuera de las previsiones del gobierno de madrid el gobierno de madrid nos dice que no hay recursos para realizar la conexión burgos gasteiz en ancho europeo en los próximos años que hay que esperar a que la situación presupuestaria mejore

moderna euskadi queda marginada una vez más centrándonos específicamente en la iniciativa que ahora analizamos

de presentar un plan detallado de inversiones de las obras pendientes correspondientes

y de ampliar el convenio de colaboración entre ambas administraciones para la construcción definitiva de la y vasca desde nuestro grupo hemos presentado una enmienda de adicción que contiene dos aspectos

y dos a trabajar seriamente por el cumplimiento de criterios y prioridades de la unión europea referidos a la alta velocidad ferroviaria

de modo que una vez construidas las infraestructuras y conectados más pronto que tarde a esta red europea nos hallemos en pie de igualdad con otros territorios de nuestro entorno

más de veinte años y por cierto señor zaballos la comisión de seguimiento del convenio se ha reunido el mes pasado recientemente y sus representantes comparecerán en esta cámara por una simple razón porque

en el último año se ha reunido más veces que en toda la época del gobierno socialista

en la comunidad autónoma en ese sentido como digo

el añadido de la nuestra besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

gracias presidenta dice el grupo socialista o más bien habría que decir reconoce el grupo

en la justificación de su iniciativa que el desarrollo de la red de alta velocidad española en ningún caso ha respondido a un ejercicio ordenado de jerarquización priorización y planificación sistemática y sistémica basada en criterios objetivos

pero queremos ir más allá y decir alguna cosa más en nuestra opinión en españa se han impulsado líneas de ave

en absoluto en muchos casos por razones exclusivamente electoralistas o clientelares es decir en españa se han producido verdaderas cacicadas

se han tomado determinadas decisiones en relación a este asunto para beneficiar a determinados partidos políticos para beneficiar a determinados poderes regionales y pensando

o electoralistas no solo se han provocado

sino que realmente se ha producido un desarrollo de la red a todas luces excesivo y en casos concretos absolutamente disparatado de hecho

dinero público de la educación de la sanidad de las políticas sociales

y de ello evidentemente como aquí se ha dicho son responsables tanto el partido popular

obrero español en nuestra opinión el gobierno de españa debería llevar a cabo una revisión a fondo de las inversiones del estado en materia de alta velocidad y debería someterse cualquier nueva inversión a estudios vinculantes de rentabilidad de necesidad

económica no podemos olvidar que estas inversiones las financian todos los ciudadanos con sus impuestos pero no todos los ciudadanos ni todas las familias

debe tenerse en cuenta analizando en cada caso si la inversión planteada es realmente necesaria algo que no se ha hecho en absoluto en españa durante las últimas décadas en muchos casos muchas de estas inversiones no han cubierto las necesidades reales de la gente han creado deuda

e incluso han creado problemas nuevos algunas obras

únicamente para favorecer determinados intereses particulares o partidarios tampoco podemos olvidar que las inversiones en alta velocidad suelen hacerse a costa

regionales de media distancia y en general se hacen evidentemente a costa del impulso de otras políticas públicas que nosotros consideramos más prioritarias más urgentes porque responde de manera más clara a los intereses generales de los ciudadanos nosotros evidentemente no queremos que se abandonen todas las inversiones aprobadas pero sí pensamos que debe revisarse a fondo la política desarrollada repitamos los errores del pasado puesto que no podemos corregir determinados dislates cometidos y actuaciones absolutamente irregulares e injustificadas se trata de al menos no repetir el despilfarro sistemático del pasado se trata en todo caso de aprender de los errores para no repetirlos el grupo socialista

francesa conocido como la y vasca y es cierto se ha producido

respecto a los plazos inicialmente planteados y plantea que realicemos al gobierno de españa dos peticiones que están recogidas en esa iniciativa que han planteado es decir de la propuesta del grupo socialista digamos que se manifiestan dos temores o dos exigencias

antes de finales del año dos mil dieciséis y que la y vasca no quede aislada respecto a las obras en euskadi

no creemos que euskadi vaya a quedar aislado y no queremos tampoco que quede aislado pero tampoco somos partidarios de instar a ningún gobierno a acelerar estas obras teniendo en cuenta la situación de crisis económica y los recursos presupuestarios

y por lo tanto se trata de dedicar esos recursos públicos a lo realmente importante y esto no se puede olvidar en un debate tan importante como este

que olvidan este asunto estamos en una situación de crisis económica el país está como está y por lo tanto se trata de destinar los recursos públicos a lo realmente importante y por eso no vamos a apoyar ninguna iniciativa que pida a este gobierno al gobierno de españa que acelere determinadas obras que nosotros consideramos que a día de hoy

es decir se trata como siempre en política de prioridades estos tramos de la y vasca pueden ser

respecto a otros tramos esto es cierto pero no pensamos que estas obras sean prioritarias respecto a otras políticas que deberían impulsarse creo que esta es la cuestión y quería preguntarles a los diferentes portavoces

a favor de esta iniciativa si ellos saben cuánto cuesto el kilómetro

sería interesante que lo pudiéramos conocer nosotros tenemos datos sobre cuánto podría costar cada kilómetro de tren de alta velocidad en euskadi digamos que para que podamos tomar las medidas políticas

indispensables y actuemos por lo tanto con rigor y en consecuencia por lo tanto la pregunta que yo les hago si saben ustedes cuánto cuesta kilómetro de alta velocidad en euskadi porque creo qué es un punto muy importante para saber si merece la pena en este momento de crisis destinar tantos recursos económicos a estas obras evidentemente la y vasca debe terminar de hacerse las obras ya se han iniciado no hay vuelta atrás y es fundamental que euskadi

recortes sociales de todo tipo se priorice el destino de los recursos públicos a algo que no nos parece que vaya a cubrir las necesidades reales que tienen

hablaba del enorme esfuerzo que han hecho los ciudadanos para impulsar estas obras por qué hacía falta tanto esfuerzo para impulsar estas obras por qué se ha hecho ese semejante esfuerzo qué cosas se han dejado de hacer para hacer estas obras esta es la pregunta merece la pena haber hecho tanto esfuerzo

obras de tren de alta velocidad especialmente fuera de euskadi en el resto de españa determinados tramos que únicamente han respondido a los intereses clientelares y partidarios

es decir que pensamos que hay otras prioridades por ejemplo el mantenimiento sin recortes de los servicios públicos esenciales

no vamos a votar a favor de nada que pretenda priorizar lo que no es prioritario ni a favor de acelerar obras que pudiendo ser importantes ciertamente lo son menos que otras políticas públicas que pensamos que el gobierno de españa debería impulsar

a favor de la transaccional que ustedes han firmado vista la transaccional

el punto número tres sí que nos parece razonable impulsar o pedir al gobierno de españa que impulse

en materia de infraestructuras ferroviarias de alta velocidad y además corregir los planes inconexos y caprichosos de la red de alta velocidad es decir que el gobierno de españa haga

por lo tanto el punto número tres nos parece el más razonable y el más sensato de entre los puntos que ustedes han incluido en esa transaccional nada más y gracias

eskerrik asko presidente andrea lehendakariak eta legebiltzarkideok egun on lo primero que voy a hacer es reconocer

a las señorías que me han precedido en el uso de la palabra por este debate que nos han brindado

no va a tener ni la mitad de efecto que el que va a tener

del apoyo unánime casi entusiasta y desde luego fraternal entre sus diferentes partidos para apoyar el tren de alta velocidad y denostar a aquellos que nunca lo hemos apoyado cierto que cuando había dinero cuando la pasta sobraba a una especie de felicitación

para reprocharse quién tiene más responsabilidad a la hora de no avanzar en los requerimientos y en los plazos

incluso se ha llegado a deslizar en las intervenciones reflexiones que nosotros venimos haciendo desde hace mucho tiempo y por las que éramos tildados de catastrofistas de apocalípticos

que la y vasca no puede ser una infraestructura que solo una las tres capitales vascas manifestando así el temor a que se quede en una especie de tren de cercanías de alta velocidad

se ha llegado a decir que no podemos estar con estas incertidumbres luego parece que el futuro

aunque nosotros ya lo manifestamos antes y llegados a este punto yo no sé si deberían seguir empeñados en esta lectura de confrontaciones en torno a ver quién es más responsable con el proyecto y con el compromiso del tren de alta velocidad si le sirve nuestra opinión que entiendo que de poco porque siempre hemos sido críticos y contrarios al proyecto de del tren de alta velocidad les diré que son igual de responsables todos

en esta catástrofe medioambiental y en esta dilapidación de dinero público que es el tren de alta velocidad así pues repártanse a partes iguales las

hagan pelea por eso sí es cierto que oído su debate

que parece que tiene ciertas dificultades pero en cualquier caso como el debate es recurrente mis argumentos

el tiempo que me queda para mostrar nuestro rechazo claro y sin matices al tren de alta velocidad a un proyecto megalómano y desde luego también lo haremos con una voluntad quizá por que todavía poseo cierta candidez pese al tiempo que uno lleva en política

que ni antes tenía rentabilidad social ni económica y desde luego respeto medioambiental ni la tiene ahora ahora mucho menos y pese a que este debate es recurrente no voy a ser yo quien desde esta tribuna utilice el símil de la película famosa el día de la marmota de bill murray porque realmente

cualquier mala secuela de los locos de cannonball en una huída hacia adelante con un destino absolutamente incierto porque eso es lo que proyectan con este debate

han cambiado las circunstancias han cambiado los

en soporte papel estoy hablando de la realidad sobre la que quería actuar y operar el tren de alta velocidad las motivaciones que se daban

para defender el tren de alta velocidad y lo curioso es que cambiando todas las circunstancias todo lo que concurría para justificar según ustedes un proyecto como este

se lo ha señalado el señor maneiro se dice que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros que van a vivir en un nivel

economía inferior al nuestro y sin embargo siguen planteando un tren de alta velocidad donde nos dicen que las personas van a poder viajar aunque carezcan de recursos y por tanto se afianza esa idea que hemos venido reiterando en más de una ocasión de que es un tren construido para unos pocos con el dinero de todos y de todas

el papel y la geolocalización que jugaba este país dentro de un modelo industrial en europa también ha variado y sin embargo se sigue pensando en un tren que ustedes me dirán que también puede transportar mercancías que siga haciendo lo mismo para un tipo de industria que cada vez existe menos y ejemplos recientes tenemos de que por desgracia cada vez existe menos ese

precisar de una red de transporte ferroviaria como la que

por tanto no existiendo esa realidad que existía cuando lo

por qué se mantiene el mismo proyecto en cualquier caso adornan siempre todo este proyecto con la dichosa

y pasamos por encima por ejemplo de que para hacer este proyecto nos hemos tenido que cargar no ya a horadar que dije en la comisión sino cargar directamente un acuífero que podría tener su valor por aquello de que el agua cada vez es un bien más escaso y de futuro

y como consecuencia de la situación descrita es decir una realidad que ha cambiado con un proyecto que permanece inalterable nos encontramos a día de hoy con las incertidumbres que seguramente son a las que hacía

es decir con que francia anuncia que no construirá hasta el dos mil treinta y dos su tramo de conexión o a la que sí se ha referido de que fomento anuncia que no construiría el tramo burgos vitoria hasta que finalice el tav y no aclara

el tercer hilo y qué es lo que proponen ustedes con su enmienda hacernos cargo nosotros de lo que no va a hacer el gobierno central así a lo bilbaíno será por dinero

ustedes señorías permítanme creo que confunden el compromiso con las personas con comprometer a las personas o con comprometer el futuro de las personas porque esta misma semana

en ausencia del alcalde de bilbao es él quien está llevando el peso de la representatividad municipal en bilbao

el metro más rápido del estado en la comunidad autónoma vasca tal cual lo he dicho literal no sé si también hay que meterlo dentro del género de las bilbainadas o era una certeza si es una certeza nos reafirma todavía más en la inviabilidad y en lo innecesario

a día de hoy sinceramente el tren de alta velocidad se parece más al tren del misterio no se sabe ni cuándo se va a poner en funcionamiento no se sabe ni cómo se va a poner en funcionamiento es decir si con tramos completos de alta velocidad o con tramos mixtos

o con francia quién lo va a poder usar cuáles van a ser los costes de mantenimiento de una infraestructura de tan alto coste y de tan alto sobrecoste

a los políticos y a las políticas se nos pide mesura sentido común y honestidad luego vienen las diferencias políticas viene

pues yo solo les voy a hacer algunas preguntas a ustedes les parece razonable que el estado español por su dimensión y por su volumen poblacional sea el segundo del país del mundo con más kilómetros de alta velocidad les parece razonable supongo que no

cualquier país de avance tecnológico industrial y poblacional

algo nos hemos pasado o algo se han pasado en el estado español con la alta velocidad y claro

me parece que no es muy razonable la segunda cuestión obedece al sentido común dilapidar dinero público en una infraestructura de nula rentabilidad

aquí no ha habido ningún estudio de coste beneficio no hay ningún estudio riguroso de coste beneficio y hay porcentajes que determinan cuándo una inversión

sostenible en términos económicos y sociales no hay ni uno para el tav y no lo puede haber porque ni siquiera con los datos previstos inicialmente era rentable pero con los sobrecostes ya ni les cuento

el infinito debate y el reiterado debate sobre si lo pagamos o no lo pagamos yo solo sé una cosa y seguro que eso lo saben ustedes conmigo señores del pnv la disposición adicional cuarta de la ley de concierto establece que a través de la encomendada gestión se pueda cargar al cupo el gasto de determinadas infraestructuras obras o servicios que preste esta comunidad y que tendría que prestar el estado eso es cierto

y si además esa disposición adicional cuarta no determina que obligatoriamente tenga que ser para el tav porque yo me la he leído y la literalidad de tiene que ser para el tav no aparece por qué no destinamos

para otro tipo de infraestructuras sociales que serían bastante más necesarias y bastante más sostenibles y sobre todo de un uso generalizado para el conjunto de la población de este país besterik ez

muchas gracias señora presidenta señor matute voy a empezar por usted que

en este pleno en este debate creo que todos las señorías que acaban de intervenir están de acuerdo en que

nadie lo ha puesto en duda lo que debatimos o en lo que no nos ponemos de acuerdo es cómo tiene que ser la forma de la gestión de las obras de la y vasca

de la catástrofe que está sufriendo y usted usted no tiene que asumir nada su partido estaba en el gobierno del señor ibarretxe cuando se iniciaron las obras de la y vasca es que aquí echamos mierda a los demás y no asumimos la nuestra propia

acabamos de presentar es que la verdad que tengo una letra que ni la entiendo ya

pensando iba al colegio con rajoy o algo en la pnl que hemos presentado

las obras se hacen cargo vía cupo por lo tanto

el gobierno vasco sino que se descuenta de la aportación que tenemos que hacer al estado y en relación a todos los temas que usted ha sacado me voy a remitir

debates que hemos tenido en esta cámara para poderme contestar a la señora iturmendi y al señor aldaiturriaga

al cien por ciento yo en mí va a encontrar la coherencia al cien por ciento

de fomento una cosa no quita la otra qué pasa porque la encomienda de gestión permite que los tramos pasen a ser

no tendremos que hacer nuestra labor parlamentaria tanto usted como yo que estamos en la oposición y controlar cómo se están gestionando esos tramos por lo tanto por qué no se puede criticar aquí

viernes la gestión que se está haciendo de los tramos guipuzcoanos perfectamente y eso es ser coherente que no confío en ganar las elecciones el partido socialista no es que no confíe es que estoy seguro que el partido socialista va a ganar las elecciones lo que usted a lo mejor ha fallado es que

y en dos mil seis era el partido socialista el que estaba gobernando en madrid

no quita para que se pueda hacer una encomienda y los tramos puedan ser asumidos por el gobierno vasco además

y esperemos que si se cumple la encomienda de gestión en ese dos mil quince

de finalizar por lo tanto aunque llegue en dos mil quince el partido socialista obrero español a madrid al gobierno espero que esta problemática se haya desatascado dice que

pues permítame que le diga que yo sí lo dudo lo dudo

cómo está actuando el ministerio de fomento y vamos a verlo

si realmente al final el nudo de bergara pasa a ser gestionado por el gobierno vasco algo que nosotros deseamos por parte del partido socialista lo vamos a ver

si usted lo sabe tanto como yo necesitan tres años para su finalización si no se licitan ya en dos mil dieciséis no estarán finalizados por lo tanto

que actúe ya y si no va a licitarlo ellos que permitan que el gobierno vasco lo licite y vamos a ver

pero del ministro montoro que también tiene que estar en este tema porque si se hace se sube el gasto

comisión de seguimiento que se ha reunido en dos mil seis mira yo no voy a ser quien saque la cara a la señora oregi pero la señora oregi ha estado detrás de la ministra mandándole cartas

por lo tanto qué vienen aquí a decir si el gobierno ha estado detrás del ministerio

y quieren ustedes dejar ver como que el gobierno socialista del lehendakari lópez no hizo nada

entre el estado y la comunidad autónoma presidida por el vicepresidente

en la cual no solo se trataba las competencias las transferencias de las competencias sino también todos los temas que afectaban

y se consiguió un acuerdo en el cual todos los meses se reunía adif y ets para desatascar el problema de la y vasca que heredamos del gobierno de ibarretxe de esa forma

que están ahora licitados por lo tanto venía a decir como que el gobierno no ha hecho nada y el señor ibarretxe desde el dos mil seis hasta el dos mil nueve que fue cuando se fueron del gobierno la señora lópez de guereñu cuando

en relación a la proposición no de ley es verdad y reconozco que el texto viene de madrid fue debatido en el congreso y fue presentado en su momento por el partido nacionalista vasco

es que señor aldaiturriaga si usted conocía esta proposición no de ley

que tuve que ser yo al ver que usted no lo presentaba quien la trajo

no tiene buena comunicación con sus compañeros del partido nacionalista vasco en madrid llame más y hablar de la gestión que el partido socialista obrero español ha hecho en el gobierno de madrid en relación a la y vasca cuando tenemos aquí

en tres años licitaron un tramo solo han licitado un tramo y no constituyeron también esta comisión

cuando la tenemos en nuestra propia casa muchas gracias eskerrik asko zaballos jauna

gracias presidenta señorías señor zaballos cuando habla usted y pone en duda de que para el gobierno de españa esta obra sea una prioridad eso son palabras palabras y estrategia política de desgaste al gobierno y yo lo puedo entender pero no es más que eso yo le he

datos la inversión realizada en dos años del gobierno de zapatero

el mandato de zapatero mil millónes de euros en el mandato del señor rajoy le recuerdo que son dos años nada más más de mil millónes de euros eso son datos objetivos incuestionables

o estrategias políticas que yo creo que nos desgastan a todos

muy complicada muy complicada porque que el que no se haya celebrado una comisión de seguimiento

no unas conversaciones con el ministerio no una comisión de seguimiento desde el dos mil seis hasta el dos mil once realmente es francamente lamentable

y además es el foro el foro para hablar para plantear para planificar para criticar y para llegar acuerdos para eso se hacen las comisiones de seguimiento

de la señora pastor para conseguir esa reunión de la comisión de seguimiento yo

hay una carta de la señora consejera pidiéndole a la señora pastor

en qué momento ocurrió recibió la ministra esa carta pues en el momento del accidente

momentos muy duros y muy difíciles y yo creo que había una voluntad como así se manifestó por parte de la ministra de tener lugar esa comisión

va a funcionar y va a sacar adelante este proyecto respecto

decirle que no tenga usted duda porque euskadi no va a quedar fuera de la conexión

no es marginación creo yo más los que nos corresponden por el cupo porque esto es solamente la parte que adif controla me hace gracia

porque ha habido una apropiación indebida podríamos decir de una proposición no de ley bueno indebida retiro

hay un proyecto prioritario que lo es para el gobierno de españa hay una comisión de seguimiento que es una herramienta colosal para llevar acabo esto

las conversaciones se están llevando acabo y hay un horizonte

de que se van hacer sin anuncios sin compromisos de fechas

lo que antes se decía que se prometía mucho pero con el dinero y sin financiación y todas esas cosas a las que nos tiene muy acostumbrado el partido socialista bueno al representante de upyd es que su discurso es tan catastrofista señor maneiro discúlpeme

es bastante catastrofista sí le respeto en el sentido de que dice que para usted no lo es prioritario tampoco

intensidad pero está en la misma línea y el señor matute desde luego cuando dice

esta sociedad quiere el tren de alta velocidad mayoritariamente quiere el tren de alta velocidad no tenga usted duda usted reflexione a quién representa y cómo está usted en qué situación está

de este país quiere el tren de alta velocidad y bueno coincido en que realmente en ocasiones esto parece el día de la marmota sí usted ha hecho esa mención yo no quería hacerla porque siempre que sale usted señor matute tengo la sensación del día de la marmota y quería huir

comentario pero como lo ha hecho usted me lo ha permitido sí me recuerda usted al día de la marmota y bueno decirles que el gobierno vasco y el gobierno de españa van hablar en esa comisión de seguimiento

estas obras y nuestro grupo el grupo popular considera que realmente más allá del juego político más allá del juego político con el que ustedes actúen

de desgaste esta infraestructura será una realidad

del gobierno de españa y mal que les pese a alguno y mal que les sonroje a otros

a algunos ya les gustaría pero no va a ser así muchas gracias eskerrik asko iturmendi andrea

con nuestro grupo parlamentario en madrid hay una perfecta aprobación no hay ningún problema lo que pasa es que usted ha andado más rápido en este asunto

usted vuelve a la carga con el tema de los porcentajes de obra realizado en la época del gobierno ibarretxe y en la época del señor lópez mire usted en esta materia yo veo que ustedes no creo quelo desconozcan sino que lo utilizan

existe lo que se llama el periodo de maduración y una vez tomada la decisión

que lleva su tiempo en esta materia hay que expropiar terrenos y hay que

es mera casualidad vamos a ver

digamos los elogios al punto número tres porque esa es la aportación nuestra a

otra más a las dos que ya constaban en el congreso de los diputados y esta tercera que es específica de nuestro grupo por tanto agradecerle sinceramente sus palabras y

hacer lo que quiera al respecto preguntaba sobre el costo del tren de alta velocidad mira según los estudios que creo que están al alcance de todo el mundo

sin embargo en euskadi esto se eleva entre veinticinco y treinta depende de algunas cuestiones y esto es debido como usted bien sabe a nuestra orografía

bendita y bonita orografía pero que dificulta y encarece

creo que es conveniente separar esto tampoco en ese sentido digamos es castilla el resto de españa en ese sentido también tiene sus especificidades respecto a bildu decir que

está claro decirles también que se pongan de acuerdo en su propio grupo porque

también está ea en su grupo votaron a favor de las infraestructuras por tanto pongase de acuerdo aunque me da la impresión de que ustedes han sido abducidos por otros

es un requisito previo para el éxito de la economía ahí diferimos con ustedes es cierto

fundamental las físicas como es este el caso y respecto a la y vasca decir que forma parte de un

que financia la unión en torno al cuarenta por ciento con previsiones de que el próximo año lo haga hasta el cincuenta tiene carácter mixto pasajeros y mercancías que lo difiere de otras redes en el resto del estado

conecta puertos y centros logísticos por vía ferroviaria y puesto que usted va de preguntas esta mañana a nosotros nos gustaría si es posible que nos contase vamos que nos respondiese a una pregunta que le voy a hacer ustedes hablan de

entre bilbao y gasteiz al día de hoy cómo piensa transportar en el medio ferroviario a las personas desde gasteiz a bilbao usted sabe o debiera saber que hoy en día se utiliza un tren que saliendo de bilbao debe transportarlos a miranda de ebro por el puerto de orduña con un trazado sinuoso que no se puede pasar de cincuenta por hora y de una sola vía

y coger otro tren hasta gasteiz es decir desandar lo andado en el mejor de los casos

señor maeztu sin embargo por carretera lo hacemos

hacía el ferrocarril como medio de transporte más eficiente por eso

y dejarse de digamos apelativos

tipo de comentario en relación a las opiniones que he planteado aquí desde upyd creo que he dicho cosas interesantes aunque a la portavoz del grupo popular

real de las cosas que se han hecho en españa en relación al tren de alta velocidad creo que no he mentido y creo que incluso ustedes pueden reconocerlo porque creo que es absolutamente cierto

se ha producido un dispendio de dinero público para acometer una serie de infraestructuras que no eran absolutamente necesarias ni prioritarias creo que esto es así es real y por lo tanto me reafirmo porque esto mismo he dicho también en otras intervenciones al fin y al cabo

señala en su propia iniciativa que el desarrollo de la red de alta velocidad española no ha respondido a un ejercicio ordenado de jerarquización priorización y planificación sistemática basada en criterios objetivos esto es lo que ha ocurrido en españa en las últimas décadas

se ha producido un desarrollo asimétrico y desequilibrado de la red esto está en la justificación

del grupo socialista pero es que no solo eso se ha producido un desarrollo excesivo es evidente que se ha producido un desarrollo excesivo de la alta velocidad en españa es evidente basada como digo en razones clientelares para contentar a determinados virreyes

allí donde gobernaban y por eso se han priorizado determinadas líneas en lugar de otras ha sido una absoluta vergüenza lo que se ha hecho con el tren de alta velocidad en españa

a la basura esto es lo que ha hecho el partido popular y el partido socialista se han cometido verdaderas tropelías se ha dilapidado dinero público se han llevado a cabo tramos absolutamente innecesarios y se han priorizado algunas líneas por intereses espurios se han producido verdaderas cacicadas en españa en relación con el tren de alta velocidad cuánto nos cuesta el kilómetro de tren de alta velocidad

veinte millónes de euros cada kilómetro veinticinco millónes de euros treinta o incluso treinta y seis en algún tramo esto también hay que decirlo señor zaballos cuando se baja a la tribuna a defender estas obras

hay que decir también cuánto cuestan para que los ciudadanos sepan si efectivamente esto se puede acometer y en el plazo que ustedes señalan quién lo paga casi me da igual si lo pagamos los vascos o no lo pagamos yo creo que hay que ser riguroso con nuestro dinero y con el dinero también del resto de los ciudadanos

los ciudadanos lo pagan todos los ciudadanos pero estas obras no las disfrutan todos los ciudadanos sino únicamente aquellos ciudadanos que pueden pagar el billete que cuesta este transporte esta es la realidad por lo tanto se han acometido obras absolutamente innecesarias

y para observar los debates que ha habido en esta cámara en los últimos meses en relación a esta materia y he encontrado una enmienda del grupo socialista que me llamó la atención

proponía que este parlamento instara al gobierno vasco y al gobierno de españa a que continúen apostando por las distintas infraestructuras puestas en marcha

entre ellas el tren de alta velocidad o el puerto exterior de pasajes bueno parece que el puerto exterior de pasajes aquello que era absolutamente fundamental y prioritario ya ha dejado de ser incluso necesario

eso que ustedes vendían como absolutamente prioritario ya no está un paso adelante y he visto también la enmienda que presentó upyd hace algunos meses y que creo que recoge perfectamente qué es lo que nosotros pensamos en relación a esta materia nosotros proponíamos que este parlamento defendiera el tren de alta velocidad como infraestructura necesaria para la mejora de las comunicaciones entre euskadi y el resto de españa y europa pero también proponíamos instar al gobierno vasco a continuar las obras del tren de alta velocidad

acompasando las inversiones en esta infraestructura a las posibilidades presupuestarias y esto que es muy importante priorizando en todo caso el mantenimiento sin recortes

esenciales creo que esto es absolutamente fundamental si tuviéramos dinero para todo quizás se podrían adelantar los plazos pero no es así

con nuestro dinero público y nosotros proponíamos que en todo caso se priorice el mantenimiento sin recorte de los servicios públicos esenciales y proponíamos al gobierno vasco también algo que es muy importante y que prácticamente nadie cita o nombra

introducir la cultura de la eficiencia en los proyectos de inversión de manera que toda inversión pública venga acompañada de un estudio realista de viabilidad social y económico financiera que la avale y justifique algo que no se ha hecho en absoluto en españa en las últimas décadas algo que ustedes no no se trata de defender las prioridades de determinados gobiernos sino de ver cuáles son las prioridades del común de los ciudadanos y también proponíamos instar al gobierno de españa a analizar de forma realista la viabilidad social y económico financiera de los nuevos proyectos de tren de alta velocidad y los pendientes de licitar y ejecutar y en fin

en esa línea por lo tanto se trata de no repetir los errores del pasado algunas cosas ya no se pueden corregir

efectivamente se trata de ser serio y riguroso con el dinero público esto no es catastrofista creo que esto es lo que esperan los ciudadanos de nosotros y efectivamente y en relación a la y vasca evidentemente debe terminarse y euskadi no debe

diciendo que nosotros no vamos a pedir que se aceleren obras que no son prioritarias

las cacicadas que ha habido en el conjunto de españa en relación también a esta materia y en relación a otras muchas materias en fin

no suspiren tanto porque efectivamente en españa se han acometido verdaderas cacicadas
y verdaderas tropelías maneiro jauna de hecho el país está maneiro jauna amaitzen joan el país está como está y

sí siguiendo el turno de las intervenciones

generación de construcciones sucesivas o de macroinfraestructuras porque ahí lo que había era especulación financiera y sobre todo beneficio de unos pocos pero nos sorprende que se diga a la vez que hay que terminar el tav el tav ha costado

y lo que habrá que ver es luego si la viabilidad de la que hablábamos antes tiene sentido o no o sea que

si va a tener sentido pero bueno más allá de eso por lo menos creo que podemos tener puntos de encuentro mayor en el debate que con el resto de formaciones

si no es que estemos abducidos si se lo ha señalado y lo señalaba el señor zaballos si yo desde esta tribuna

le podrán señalar cómo incluso había una cláusula dentro del acuerdo de gobierno

con el tav algunos de los que están aquí la conocen por activa y por pasiva y usted

posible y en cualquier caso le diré lo mismo que usted y compañeros de bancada suya dicen muchas veces aquí lo que estamos haciendo es cumplir el programa no hay cambio de posición lo que estamos haciendo es cumplir el programa de euskal herria bildu que es muy claro muy tajante con el tren de alta velocidad

y me hacía una pregunta me decía cómo mejorar el transporte entre las capitales

mañana nos ponemos de acuerdo si su verdadero problema es cómo conectar gasteiz con bilbao y cómo conectar las capitales de forma más adecuada mañana nos podríamos poner de acuerdo pero usted sabe que ese no es

porque si lo supiera si estuvieran dispuestos siquiera a variar su posición

que determina mejores modos de conexión y de menor devastación ambiental y de menor impacto económico que

mucho me temo respecto a la representante del partido popular si yo no he dicho que este debate me parezca el día de la marmota he dicho que un representante de su partido en este caso el señor sémper suele hacer alusión en muchas ocasiones a esa película pero bueno en cualquier caso no me molesta que yo a usted le recuerde el día de la marmota verá

mucho más excitante y mucho más eléctrica que esta que me depara para mí sí le diré para que en posteriores debates no tenga que lanzar el anzuelo a ver si pico que mi simpatía por una isla por cuba sigue intacta

el discurso típico y tópico del muro de berlín los cascotes y el comunismo que el señor barrio

más allá de eso señalarle al representante del partido socialista una cuestión es decir nosotros cuestionamos todo el trazado de alta velocidad no solo por su viabilidad sino por lo que esconde detrás porque esconde la apuesta por un modelo desarrollista que no progresista

ese modelo se ha sostenido mientras no se ponían en cuestión los límites finitos del planeta pero en cuanto los límites finitos se han demostrado como tales finitos mantener

desde nuestro punto de vista una obscenidad y más desde la izquierda y se lo digo esto sí con un tono de mayor seriedad que el que he empleado hasta ahora en la intervención porque a nosotros nos podrán decir lo que quieran

primitivos que queremos el no progreso y ahora viene lo de la película que estamos en contra que estamos en contra de la modernidad y ustedes apuestan por un modelo que crea aeropuertos sin aviones carreteras sin coches vías

más que de cualquier otra cuestión pero en cualquier caso sí le diré que me parece

que seamos capaces todos de ver la indecencia de construir macro infraestructuras que no servían para nada pero que se justificaban en no sé qué necesidades como por ejemplo el aeropuerto de castellón y que ahí incluso seamos capaces de comentar por activa y por pasiva que ante el despropósito poco menos que tendrían que pasar por el juzgado

es lo mismo el despropósito para el beneficio de unos pocos eskerrik asko matute jauna

konparatzen badugu este nuevo plan funcional que nos fue presentado el veintidós de mayo en la comisión de sanidad y consumo que fue presentado no por el consejero la petición concreta iba dirigida al consejero pero lo presentó el viceconsejero de sanidad director de asistencia sanitaria luego el consejero se disculpó y este grupo que fue el que solicitó dicha comparecencia

disculpas digo que este plan contemplaba una única organización asistencial de atención a los pacientes con patologías agudas

con recursos asistenciales en las dos sedes en el hospital de txagorritxu y el hospital de santiago después

que llevaron a concluir que el ejecutivo estaba elaborando o

el veintidós de mayo al que acabo de hacer referencia por un lado después de la comparecencia del viceconsejero y del director de asistencia sanitaria el veintidós de mayo

comparecieron también en la comisión de salud y consumo concretamente los jefes de servicio de especialidades como pediatría neumología oncología cardiología neurología y anestoriología

esta comparecencia se sustanció el veintiséis de junio concretamente cuestionaron y criticaron aspectos concretos del reparto de especialidades entre las dos sedes entre los dos centros y cuestionaron y criticaron concretamente que

especialidades de otras con la división que se había hecho en la de ese plan funcional y que chocaban claramente con la idea de impulsar una atención un modelo integral de atención sanitaria en el territorio

no tenía mucho sentido posteriormente todos también

el veintiséis de septiembre concretamente el partido nacionalista vasco y el partido socialista suscriben un acuerdo concreto dicho acuerdo se hace referencia también a este hospital por lo tanto ese plan funcional que se nos presentó el veintidós de mayo en comisión

y concretamente yo creo porque el plan funcional presentado fue

en sus aspectos fundamentales y en el reparto de las especialidades y que eso chocaba con la intención

en el plan funcional originario presentado la legislatura pasada y que este grupo además compartió

presentamos varias enmiendas a lo largo de los presupuestos de la pasada legislatura

incrementando las partidas inicialmente previstas digo que sobre todo la crítica de estos

en el reparto entre las dos sedes cuestionaron este plan funcional y eso yo creo que llevó al ejecutivo a plantearse el plan funcional presentado este grupo

alguna pregunta oral en pleno también algún grupo con representación en esta cámara y en una respuesta concreta el consejero nos decía que estaba en relación a cuándo se remitía el nuevo plan funcional del hua

algunos aspectos del presentado por las críticas y los aspectos cuestionados del mismo se nos decía que estaba previsto que el plan funcional del hua se presentara en ambas sedes a lo largo del mes de octubre

el plan director se iniciará una vez finalizado el plan funcional y previsiblemente podrá ser presentado

dos mil catorce nosotros sí sabemos y tenemos conocimiento de que este plan funcional digo el modificado ha sido presentado en las sedes de txagorritxu y santiago

que a día de hoy independientemente de que haya habido contactos informales y al margen de la sede parlamentaria y que este grupo

los ha agradecido y así se lo ha trasladado al consejero donde se han explicado aspectos

se estaban desarrollando los acontecimientos en relación a los cambios en el plan funcional digo que en este parlamento no tenemos

de la remisión de ningún plan funcional al margen de la comparecencia que se produjo el veintidós de mayo quiero decir que para este grupo y por respeto a esta cámara parlamentaria teniendo conocimiento de que hay un plan que se está presentando y que está siendo sometido a la consideración de los distintos especialistas creo que por mera cortesía parlamentaria hubiera sido conveniente que este plan hubiera sido remitido parlamento y más teniendo en cuenta cuando se nos contesta en esta pregunta claramente que se ha presentado en las dos sedes en el mes de octubre y que en el mes de enero va a estar el plan director quiero decir que ya es que estamos finalizando el presente año al principio del próximo ejercicio se nos dice que va a ser presentado el plan director y esta cámara no tiene conocimiento

o las modificaciones producidas en el plan funcional presentado como digo en mayo el partido nacionalista vasco y el señor tellería me va a decir

el consejero ha solicitado la comparecencia correspondiente

no ha podido sustanciarse y yo creo absolutamente y desde este grupo consideramos absolutamente oportuno que sea remitido el plan funcional y más cuando hace ya mucho tiempo que no tenemos noticias en relación a este proyecto en este parlamento mas

a principios del curso va a ser presentado el plan director y por lo tanto creemos conveniente

no de ley que insta al gobierno vasco a remitir a la mayor brevedad posible al parlamento vasco

funcional para el partido popular desde luego es un plan y es un proyecto absolutamente estratégico el proyecto del hospital universitario de álava

que fue diseñado como decía al principio de mi intervención en la pasada legislatura que fue diseñado en profundidad

proyecto de estas características es dinámico y puede estar sujeto a cambios porque hablamos de construcción de dotaciones sanitarias específicas

y con una cuantificación en los presupuestos también plurianual y desde luego no

nosotros apoyamos ese proyecto creo que en la medida de nuestras posibilidades lo impulsamos y además como decía anteriormente

enmiendas como recordará bien el partido socialista y el lehendakari también aquí presente para incrementar las partidas inicialmente previstas

que sustentan este proyecto estratégico creemos en que haya una respuesta de hospitalización a las necesidades de pacientes agudos

nosotros abogamos por la construcción de una infraestructura específica pero sin lugar a dudas hoy defendiendo que las necesidades o seguimos hoy afirmando que las necesidades de hospitalización de los enfermos crónicos en vitoria está sin resolver y que los enfermos crónicos

y que en los territorios vecinos ya hay infraestructuras específicas para crónicos tanto

estar al mismo nivel en lo que se refiere a la atención de enfermos crónicos en la ciudad de vitoria otra de las premisas que seguimos apoyando es la reordenación y ampliación de la oferta asistencial en álava con mejoras

van a posibilitar aumentar la capacidad resolutiva y la efectividad clínica se hablaba en el proyecto diseñado y se contemplaba específicamente un edificio de consultas externas gracias al impulso que se dio a lo largo de la legislatura aunque haya sido este gobierno

lo haya inaugurado pero este proyecto se ejecutó mayormente en la pasada legislatura

ha visto la luz pero también se contemplaban en el proyecto de la reordenación sanitaria en el territorio histórico de álava otras infraestructuras otras dotaciones que nosotros creemos

económicamente en ese sentido también este partido ha presentado una enmienda a los presupuestos incrementando la partida o las partidas inicialmente previstas en relación

rechazada pero esperemos que ya con la dotación prevista en los presupuestos este proyecto siga adelante se hablaba

de investigación biosanitaria del bloque técnico de un edificio materno infantil es decir se hablaba de infraestructuras absolutamente necesarias para

asistencial y tener equipos más dimensionados y más competitivos por eso consideramos que sigue siendo oportuna esta iniciativa al margen que el consejero haya solicitado a la comparecencia correspondiente que además

ya posiblemente en el mes de febrero sería conveniente que nos vayan ustedes proporcionando

las modificaciones que ha tenido ese nuevo plan funcional presentado en el mes de mayo y que así además nos podamos poner al día en esta cámara y que incluso

consejero que esperamos también por parte de este grupo que esta vez sí venga el consejero y dado que también ha solicitado la comparecencia también como la vez anterior

avanzado a mí me da la sensación de que en algunos aspectos relacionados con este proyecto hay ciertos oscurantismo o indeterminados momentos hay una cierta indefinición imprecisión

trayendo el plan a esta cámara el plan solicitado de que haya más transparencia y que tengamos esa información que desde luego en el grupo popular la consideramos absolutamente necesaria para conocer de primera mano

cuál es el estado real de este proyecto en este momento en territorio histórico de álava y que lo consideramos tan importante espero que la iniciativa

la solicitud pues es de sentido común y es oportuna y en ese sentido

pues los grupos la consideran oportuna también nada más muchas gracias eskerrik asko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd zurea da hitza maneiro jauna presidenta únicamente para decir que votaremos a favor de esta iniciativa

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den roncal andereak dauka hitza sí señora presidenta si me lo permite desde el escaño

los buenos días a todos los presentes en la cámara y para señalar que por supuesto que vamos a apoyar de un modo absoluto esta propuesta que nos hace el partido popular

desde nuestro punto de vista consideramos que significa una falta de deferencia con el parlamento y si se me permite de respeto

hacia quienes representamos a los ciudadanos dado que hemos considerado en este parlamento este plan estratégico para la atención sanitaria en álava y que llevamos trabajando

nos sorprende que la nueva situación del plan funcional que todavía no conocemos puesto que el que se nos presentaron en mayo tuvo una crítica política y profesional

del pnv con el partido socialista se ha

que siempre ha defendido el gobierno que lo quiere hacer con el consenso dónde está la posibilidad de participar en el consenso y las aportaciones desde este parlamento por eso mismo ha habido ya varias iniciativas parlamentarias pidiéndole al consejero su presencia en la comisión de sanidad

es posible que no toda la responsabilidad de la no comparecencia del consejero se le tenga que achacar a él pero sí es cierto que podía haber tenido una iniciativa

al objeto de poder preparar la futura comparecencia que ya vemos que hasta febrero no va a poder tener lugar la pregunta que nos hacemos es

unas explicaciones y un plan funcional que no responde exactamente a lo que tanto habían predicado en campaña electoral y a unas críticas de trazo

y al plan funcional presentado por el gobierno socialista que ahora se ha visto de alguna manera refrendado puesto que era un plan racional muy meditado y que efectivamente como se ha señalado aquí permite mejoras modificaciones porque la vida es así es dinámica y existen siempre posibilidades de mejora cosa que le concedemos al gobierno que las presente y las aporte por lo tanto

el respeto al parlamento el respeto así mismo al propio consejero en su voluntad de consenso político a este nuevo plan así como la posibilidad de participación del parlamento por tanto

la iniciativa que nos parece oportuna del partido popular

la situación de que desconocemos cuál es la prioridad de inversión que tiene

por tanto que venga cuanto antes el plan funcional y que nos permita la participación política
a este parlamento nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal andrea